gracias presidenta buenas tardes a todos lo cierto es que el día

casi tres años y medio nosotros presentamos una iniciativa la reforma de las relaciones de los puestos de trabajo en la administración pública vasca en lo referente a los perfiles lingüísticos en aquella iniciativa registrada como digo el pasado día seis de noviembre del año dos mil nueve lo que planteábamos instar al gobierno vasco a la reforma de todas las relaciones de puestos de trabajo de la administración pública vasca revisando las exigencias de los perfiles lingüísticos de tal manera que estos perfiles lingüísticos se adecuaran a las exigencias y a las necesidades de la prestación del servicio de tal forma realicen con una valoración exclusivamente técnica y no con criterios políticos como se han hecho durante los últimos años esta es

el once de febrero del año dos mil diez y ante esta iniciativa digamos por resumir de upyd

lo cierto es que los grupos del partido popular y del partido socialista de euskadi que en aquella época tenían mayoría absoluta en esta cámara firmaron

esta iniciativa original que nosotros planteábamos en esta enmienda de transacción que el grupo socialista y el grupo popular firmaron se instaba

de la administración pública vasca en función de las necesidades del servicio de la demanda en cada zona y de la necesidad de garantizar el derecho a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la cap es decir en aquella transaccional que el grupo socialista firmó con el

no pedían revisar los perfiles lingüísticos no pedían reformar sino únicamente pedían al gobierno vasco analizar y nosotros dijimos en aquel debate

estos perfiles lingüísticos tienen que adecuarse realmente a lo que cada puesto de trabajo necesita

era la época en la que upyd proponía iniciativas contra las imposiciones lingüísticas

y el grupo popular y el grupo socialista se unían para que estas iniciativas no salieran

transaccional fue aprobada el día once de febrero del año dos mil diez nosotros el veintisiete de julio de ese mismo año realizamos una serie de preguntas

preguntábamos básicamente a la consejera si el gobierno vasco había ya realizado el análisis de idoneidad de los perfiles lingüísticos asignados en las rpt

era lo que se le pedía al gobierno la respuesta consejera respuesta recibida en el año dos mil diez en concreto el día veintidós de septiembre del año dos mil diez decía lo siguiente el análisis de idoneidad de los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo de la administración pública vasca se realizará del año dos mil once pues bien estamos ya en marzo del año dos mil trece y ese análisis sigue sin realizarse es por ello que nosotros volvemos a traer la misma o parecida iniciativa para volver a pedir al gobierno

que analice las rpt en lo que se refiere al perfil lingüístico pero que no solo analice sino que reforme todo aquello que sea necesario

a los ciudadanos se les exija un perfil lingüístico en euskera o se le exija euskera únicamente cuando el trabajo que

necesita de los conocimientos del euskera este es en resumen propuesta que nosotros realizamos dos años después lo cierto es que el día veintisiete de marzo del año dos mil doce la consejera de cultura

sobre la materia reconoció que el análisis cualitativo de idoneidad de los perfiles lingüísticos no se había producido todavía

que se produjera antes de finales del año dos mil doce por lo tanto se pedía en esa transaccional el análisis de las rpt en un primer momento se nos dice

dos mil once podrían realizarse y posteriormente se nos responde

del año dos mil doce se realizarían pues bien insisto en marzo del año dos mil trece siguen sin realizarse esos

esta proposición no de ley de cuatro puntos que dice lo siguiente por un lado instamos al gobierno vasco a presentar ante la comisión del parlamento competente en la materia

de los perfiles lingüísticos e instamos al gobierno vasco a reformar todas las relaciones de puestos de trabajo de la administración y de su sector público en lo que se refiere

dichas exigencias se adecuen a las necesidades de la prestación del servicio

será exclusivamente técnica y no seguirá criterios políticos tercer punto que mientras no se proceda a la reforma antes citada no se convoquen ofertas públicas de empleo

salvo en casos de extrema urgencia y necesidad y finalmente en el cuarto punto proponemos que de forma general en los diferentes procesos selectivos de personal al servicio de la administración general de la capv y de su sector público se exima de la acreditación de perfil lingüísticos para poder presentarse a las plazas cuya fecha de preceptividad

rpt la valoración como mérito de los conocimientos de euskera no supondrá el menoscabo de la puntuación correspondiente a los méritos profesionales o académicos

a este cuarto punto se trata de que para puestos que no tienen perfil lingüístico asignado para aquellos cuya fecha de preceptividad no está vencida

en los que esa fecha no se ha definido se reconozca de forma práctica lo que es un hecho que el conocimiento del euskera no es necesario para un buen desempeño del trabajo estamos hablando en definitiva de centenares de ciudadanos vascos que han venido realizando su trabajo y para realizar perfectamente su trabajo no han necesitado saber euskera y esta es por lo tanto la exigencia que nosotros volvemos a plantear por lo tanto como decía al principio una proposición no de ley justa

y por lo tanto espero que todos aquellos grupos políticos que estén a favor de la libertad y contra la imposición lingüística

finalmente voten a favor de nuestra iniciativa nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda

izan daitezen somos lo que décimos y hacemos al decir ya que el uso lingüístico es un espejo fiel de la identidad socio cultural de las personas euskara

desorekatua dagoena orekatzera jo behar dugu pedimos un trato de igualdad es decir conseguir en toda euskal herria el mismo estatus de igualdad y situación de paridad

en el campo político jurídico y sociolingüístico con el que cuentan tanto el castellano como el francés en sus respectivos estados euskal hiztunak

con el desarrollo integral del euskara ganamos todas y todos tanto las personas vascoparlantes como las que no lo son

mil ochocientos tres castigos corporales por hablar euskera en la escuela mil ochocientos cincuenta y siete obligatoriedad de la escolaridad solo en castellano mil ochocientos sesenta y dos

mil novecientos dos orden que castiga a los maestros que enseñan en su idioma o dialecto mil novecientos veintitrés

mil novecientos veinticinco se retiran los libros de texto en euskera y suspensión de empleo y sueldo a quienes enseñen en esa lengua

mil novecientos cuarenta y cuatro prohibido el euskera en las escrituras públicas mil novecientos cuarenta y ocho prohibido el euskera en las escuelas mil novecientos cincuenta y cuatro prohibido el euskera en la radio mil novecientos sesenta y cuatro prohibido el euskera en discos y en publicidad

bueno yo creo que sobre temas de política lingüística creo que tenemos que fundamentarnos en dos principios básicamente

y le puedo decir que la relación de puestos de trabajo es un sistema complejo que tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana si no se hacen en base a criterios y sobretodo a informes y estudios que como usted muy bien

están todavía por venir a la cámara están todavía por ser terminados algunos de ellos en ese sentido la enmienda transaccional que mi grupo ha firmado con el grupo nacionalistas vascos

tiene que venir el informe de evaluación del grado de cumplimiento del plan de normalización del euskera para el periodo dos mil ocho dos mil doce

está previsto para este primer cuatrimestre del año tiene que venir a la cámara también el estudio de idoneidad de los perfiles lingüísticos que yo creo que ese es una aspecto clave para abordar este tema de las relaciones de los puestos de trabajo

los perfiles lingüísticos y por lo tanto esto hay que verlo en un contexto y sobre todo no piense usted yo creo que asignación de perfiles lingüísticos se hace en base a criterios arbitrarios se hace siempre en base a criterios normados

compuesta por técnicos del gobierno vasco que son los que en base a normativa vigente y con el mapa sociolingüístico en la mano son los que establecieron en su momento los perfiles lingüísticos a las plazas el perfil lingüístico es un requisito más

yo creo que tenemos que tener también en cuenta el estatuto de autonomía la ley de normalización de uso del euskera y no olvidarnos que estamos en una comunidad bilingüe que la administración

tiene la obligación de utilizar la dos lenguas las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en el puesto de trabajo

y como le digo quienes establecen en cada momento y quienes analizan es una comisión que sigue un procedimiento absolutamente tasado y regulado

usted repite en su proposición no de ley la idea del innecesario conocimiento del euskera lo ha repetido en algunos párrafos yo ahí discrepo yo creo que el conocimiento del euskera en la administración

debe de serlo y la mayoría de los puestos de trabajos tienen perfil lingüístico y por lo tanto el tema es además

euskadi no es la euskadi del año mil novecientos setenta y nueve sino que estamos en el año dos mil trece las generaciones son masivamente bilingües

de las generaciones en el uso del euskera es cada vez mayor

hay que reconocer que en el año dos mil veinte podremos observar seguramente con acierto algunas de las medidas que se han tomado en los últimos años en ese sentido el decreto de convalidaciones de los títulos de euskara o el decreto

según a qué nivel esa es la acreditación que acreditarán

a las oposiciones usted dice que reitera que no es necesario el uso del euskera y yo le puedo decir

y además le voy a unir dos criterios uno el criterio de la necesidad en los puestos de trabajo

económica en la pasada legislatura unimos ambos criterios y por primera vez la administración vasca tuvo un punto de inflexión y unimos además un criterio de ahorro económico en el coste que todos los departamentos tenían en traducciones

utilizar los servicios propios centralizamos el servicio de traductores existe una política unificada de traducción en el gobierno desde el año dos mil once

los funcionarios tienen que usar el euskera en su puesto de trabajo si el perfil así lo exige

el trabajo diario los documentos diarios estandarizados se hacen en euskera y se hacen en euskera porque si los mandan a traducir se les va a cobrar el precio más caro que tenga el iva y por lo tanto

con el criterio de uso de las traducciones yo comparto con usted y mi grupo comparte con usted la necesidad de revisar los perfiles lingüísticos hay determinados puestos que no deban de tener el perfil cuatro para la tarea que desempeñan

que se tenga que decidir de una manera ligera sino que tiene que ser en base a un sesudo estudio de los informes que nos vengan del gobierno

sociolingüística de la realidad de las necesidades de la administración y de la labor que desempeñan cada uno de los trabajadores públicos en su puesto de trabajo

yo creo que primero de todo esperar que el gobierno nos haga llegar esos documentos que se analicen y después de analizados se tomen las decisiones pero siempre en base a criterios normados y creo que hay que

mejor conocen las necesidades de la administración para saber

y cuál es el perfil más ajustado nada más y muchas gracias eskerrik asko

la actual exigencia de los perfiles lingüísticos asignados en las vigentes rpt

bestetik gaur egun indarrean dauden lanpostuen zerrendak direla eta legez bestekoan honako hau esaten duzu las relaciones de puestos de trabajo determinan de manera inadecuada

señora presidenta señorías buenas tardes bien efectivamente como decía el señor maneiro hay algunas asignaturas pendientes de la pasada

legislatura en relación con esta cuestión y esta es una de ellas

realismo a la asignación de perfiles lingüísticos en la administración

eliminar algunas de las dificultades e ineficiencias detectadas

lingüístico y hacer que la necesidad que la objetividad fueran las condiciones exigidas y no en determinados casos la imposición o la desproporción de la que se ha hablado también

mi grupo durante muchos años ha pretendido en esta cámara racionalizar y reorientar lo relativo a la implantación y gestión de los perfiles lingüísticos pero señor maneiro le aseguro que con poco éxito a lo largo del tiempo incluso en la pasada legislatura usted mismo

para analizar la idoneidad de los perfiles lingüísticos en función de las necesidades del servicio de la demanda en cada zona y la necesidad objetiva de relacionarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales pues bien

pero el gobierno tuvo tiempo de hacerlo porque usted ha recordado cuando se aprobó pero no lo hizo no lo hizo y acabó la legislatura y el gobierno socialista no encontró oportuno hacer ese análisis que nosotros también le exigimos

no cumplió las exigencias que se firmaron en el documento de bases firmado por los dos partidos al inicio de la legislatura anterior en relación con esta materia

sobre un cambio en la gestión de la política lingüística ligada a la administración y a los empleos públicos y a las opes pero el gobierno incumplió el acuerdo y no hizo nada no hizo absolutamente nada seguimos estando

con abordar esta cuestión álava bizkaia y gipuzkoa y sus respectivos municipios con sus comarcas sus cuadrillas

funciones públicas no significa que en cualquier sitio en las que se vayan a llevar a cabo requieran la misma capacitación lingüística bueno de eso hemos hablado muchas veces y está muy claro señor maneiro

minoría en la cámara los que queremos modificar la aplicación de los perfiles lingüísticos en los puestos públicos atendiendo a criterios de ubicación de necesidad de

y que entronca con lo que mi partido ha defendido en esta cámara siempre entiendo que

también para nosotros y fue un claro incumplimiento del gobierno anterior y para finalizar y como he dicho la política lingüística y en este caso los perfiles lingüísticos

a esos criterios de realismo de necesidad de objetividad que hoy

es complicado es muy complicado pero voy a ver si consigo que ustedes entren en razón

escuchen los argumentos y no desvíen la atención hacia otros temas cercanos pero que no son de los que estamos hablando

sea necesario saber euskera para poder atender a los ciudadanos que quieren relacionarse con la administración en euskera y otra cosa es imponerlo

entienden esto ustedes o no lo entienden una cosa es defender el fomento del euskera

de imposición lingüística son cosas distintas por eso digo iniciativa contra el talibanismo lingüístico contra las políticas de imposición lingüística y a favor

no cuestionamos ni atacamos el euskera sobra decirlo no deberíamos decirlo estamos cuestionando determinadas políticas lingüísticas

en euskadi contra miles de ciudadanos que no

en la administración entienden esto ustedes o no de esto se trata la representante de eh bildu hablaba de los dislates cometidos contra el euskera durante el franquismo efectivamente se cometieron disparates absolutos contra el euskera y se vulneraron derechos lingüísticos por supuesto que sí

ahora estamos hablando de las imposiciones del siglo veintiuno para imponer el euskera a miles de ciudadanos y le repito lo que yo en una pregunta

hablando sobre este asunto y le recordaba casos concretos ejemplos concretos y le decía

conocimientos lingüísticos en euskera cuando el conocimiento del idioma no es en absoluto necesario para realizar perfectamente su trabajo profesores sustitutos a los que se les exige saber euskera para dar clases de un idioma extranjero en el modelo a profesores sustitutos a los que se les exige saber euskera para dar clase de lengua castellana

profesores a los que se les exige saber euskera para dar lengua y literatura española asignaturas impartidas en castellano asignaturas impartidas en lengua extranjera y clases de idiomas

con el título de ruso cursado en españa que no puede apuntarse ni a listas de sustitución para dar clases de ruso en la escuela oficial de idiomas ya que no sabe euskera

son casos concretos son vulneraciones flagrantes estamos hablando de un director de orquesta que compareció por cierto en la comisión correspondiente un director de orquesta con amplia experiencia y conocimientos contrastados por alumnos y padres que perdió su empleo por no saber euskera cuando nunca lo necesitó para ejercer perfectamente su trabajo y multitud de funcionarios

que ocupan plazas con perfil lingüístico sin fecha de receptividad o con fecha no vencida

presentarse el día que esa plaza salga a concurso a pesar de que vienen realizando su trabajo perfectamente de estos casos concretos estamos hablando de miles de ciudadanos que se han tenido que ir de euskadi porque se les ha querido imponer una lengua como se hizo antes

en contra de los derechos lingüísticos de personas que querían expresarse en euskera estamos hablando y esto no creo que sean razones técnicas de una mujer

a la que se le exige para poder seguir trabajando como auxiliar de cocina perfil lingüístico y que no puede ni siquiera presentarse por razones que ustedes comprenderán ocurren están ocurriendo no estamos hablando de mil novecientos veintitrés estamos hablando de dos mil trece son casos concretos miles de ciudadanos vascos que están viendo sus derechos vulnerado quieren ustedes esto o no de esto es de lo que estamos hablando esta situación por lo tanto está provocando discriminaciones lingüísticas vulneraciones de derechos miles de personas que conocemos aquí perfectamente compañeros nuestros amigos familiares que han tenido que irse

para desarrollar un trabajo que lo podían hacer perfectamente bien sin saber euskera de eso estamos hablando de imposiciones lingüísticas contra ciudadanos

y después vengan a hablar por lo tanto estamos hablando de derechos estamos hablando de personas que lo han pasado ciertamente mal durante demasiado años efectivamente ahora se nos plantea otra enmienda de transacción en la que se vuelve a pedir al gobierno

en febrero del año dos mil diez dónde está este análisis qué ha hecho el gobierno socialista durante todos estos años nada no ha hecho nada y este gobierno hará todavía menos dónde está ese análisis es que además no se trata de presentar ese estudio o ese análisis se trata de decir

no se pueden exigir conocimientos lingüísticos excesivos a personas que no

hace ochenta años sino de lo que ocurre ahora de miles de personas que han tenido que irse que han perdido sus puestos de trabajo o que no pueden acceder a determinados puestos de trabajo

por lo tanto en definitiva insisto para terminar una proposición no de ley contra el talimanismo lingüístico contra la imposición lingüística

galde egin dit es una niña erantzun diot eso no importa para los papeles es lo mismo

que me ha precedido en el uso de la palabra sobre todo al proponente y al representante del grupo popular que hacer un

ni fácil ni se puede pretender que se haga en poco tiempo es verdad que se

que esuna tarea que tienen que acometer todos y cada uno de los departamentos del gobierno todos y cada uno de los organismos autónomos trasladarlos a política lingüística y por lo tanto es por lo que

este estudio y es por lo que pedimos que venga a la cámara en cuanto a que el gobierno socialista no hizo nada yo discrepo señor barrio creo que hicimos

es verdad que es un camino lento pero el gobierno moduló la exigencia del euskera en las ofertas públicas de empleo dentro de la legalidad vigente y consiguió algo

pero que lo voy a repetir y es que quien tiene el perfil lingüístico acreditado que lo use es decir que no asistamos

a una cuestión que la verdad es bastante paradójica que es el doble gasto me acredito el perfil me saco el perfil muchas veces

es un derecho de los trabajadores públicos acreditan el perfil con cargo a presupuestos públicos y luego además nos encontramos con la paradoja de que una vez

y la administración se ve obligada a asumir un gasto de traducciones por primera vez el gobierno vasco tiene una política de traducciones oficiales y por primera vez el que tiene el perfil acreditado trabajará en euskera en su puesto de trabajo como utiliza

yo creo que el análisis de los perfiles lingüísticos vendrá y podremos acometerlo deberán analizarse y ordenarse para responder a las necesidades actuales del puesto de trabajo pero también tendremos que hacer una proyección o deberá hacerla el gobierno con las necesidades futuras porque también

la relación de puestos de trabajo y la función pública es un ente bastante complejo que tiene varias piezas

y por lo tanto si vamos a tener una ley de función pública vasca donde la movilidad de los funcionarios va a estar contemplada en la misma tendremos que darle la versatilidad suficiente como para que ese perfil lingüístico que tiene ese señor

le sirva para estar en varios puestos en función de las necesidades del momento del gobierno por lo tanto es una tarea que hay que acometer con tranquilidad con serenidad en base a criterios

pero también teniendo en mente qué administración vasca queremos para el futuro y qué trabajadores públicos necesitamos a la altura de las circunstancias para esa administración vasca del futuro para que nos facilite esas tareas que también son de pura lógica y que la eficiencia económica nos ha demostrado que son necesarias que es la movilidad de los trabajadores porque a veces nos encontramos con servicios que están mirando prácticamente y con otros servicios que están absolutamente saturados y tenemos las manos atadas y yo creo que la administración tiene que pensar en todas esas cuestiones que hace treinta años
pues la verdad no se planteaban nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko presidente andrea el artículo cuarenta y dos del decreto ochenta y seis barra noventa y siete

pues estaría exenta del cumplimiento de los perfiles lingüísticos según ese artículo eta gainera gero aipatu duzu errusiako filologo bat

galdetuko lizuke podría ser profesora de ruso en una escuela oficial de idiomas si esa persona no supiera castellano besterik ez

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta desde el escaño con su permiso bien nosotros
estamos de acuerdo con el toque de atención que quiere ser esta proposición no de ley que presenta el señor maneiro yo creo

se perdió una oportunidad de racionalizar y de adecuar un planteamiento

de gobiernos anteriores y sí se incumplió una posibilidad de cambio que debió de moderar un escoramiento constante hacia la imposición y sobre todo hacia el desaliento de tantas personas que vieron frustradas muchas expectativas por una cuestión

que no iban a tener que utilizar en su vida como sabemos y hoy podemos

esa posibilidad perdida de moderar y de racionalizar hemos perdido esa oportunidad pero bueno nosotros seguiremos

como en la calle ya sea adhiriéndonos a las manifestaciones y demandas como las de este sábado

o el próximo sábado también en bilbao convocada esta por el gune social o también para mostrar

que permanecen en la iglesia san francisco de asís del barrio zaramaga animo zuek

caf cinfa cementos lemona corrugados de azpeitia holtza eusrest laminaciones arregui panda

herri eta bizitza duin baten aldeko borroka porque la situación que viven estos trabajadores y trabajadoras vascas no es fruto de la casualidad no es ni siquiera fruto de la mala gestión de sus empresarios hay una lógica detrás de esa situación y es una lógica perversa la lógica capitalista

señalaba que el propio sistema capitalista organizaba un excedente de trabajadores al que llamaba ejercito industrial de reserva este excedente

cuanto mayor es el número de personas desempleadas cuanto mayor es el número de personas que necesitan de un salario para garantizar su supervivencia

facilitar el despido y degenerar las condiciones laborales de toda la clase trabajadora y por eso hoy nos resultan tan habituales inquietantes términos como despidos y reformas pero estos no son el síntoma de una crisis son en todo caso la constancia de un robo programado a gran escala

como los tienen las víctimas a muchos de ellos les citamos cuando citamos a sus empresas otros obedecen a nombres concretos como jose antonio diéguez vecino de bilbao que se arrojó por la ventana

por qué los recortes son siempre en salarios en prestaciones sociales en sanidad en educación en el núcleo duro de las políticas sociales y nunca en ayudas bancarias

por qué se han aplicado tantas reformas laborales para conseguir tan poco fruto porque cuál es el guión de las reformas laborales

deben dinero a los bancos los bancos a su vez en plena crisis de liquidez exigen la devolución de este dinero para ello acuden todos juntos al presidente de turno sea este rajoy

y lo hace rescatando a los bancos con dinero público o con reformas laborales que facilitan el despido los cierres

esa es la realidad junto a esto el desmantelamiento del sistema de pensiones

y la educación el copago el adelgazamiento de las prestaciones sociales junto a la criminalización de las personas perceptoras y un largo etcétera de medidas que solamente tienen una víctima las clases populares han logrado ya que tengamos más de ciento setenta y ocho mil parados en la capv todo un récord enhorabuena han conseguido que casi la mitad de ellos

estén en paro y sin prestación alguna que percibir enhorabuena también por ello

y han conseguido además que el noventa y dos por ciento de los contratos sean contratos temporales y no indefinidos que era el objetivo

que decide reducir y hacer añicos una demanda histórica del momento sindical como el de las treinta y cinco horas y nos hablan de daños colaterales en este caso de varios miles de daños colaterales

con la aceptación acrítica de devolver a la mujer al hogar y con la

desde toda su vida pero empleo remunerado no condiciona

obtenerlo esas son las recetas que se nos están poniendo encima de la mesa y esos son los duros datos de la sumisión del ajuste la deuda y la reducción del déficit qué es austeridad o austericidio

beste herriekiko erreferentzia bihur daitekeena y porque poco tienen que ver la clase trabajadora de este país

y al sobre es posible iniciar un camino diferente sí

esa es la triste realidad desde cerca ustedes señores del partido popular han conseguido

han conseguido destruir tanto empleo que hasta su propio tesorero

en cualquier caso como le decía es posible iniciar o les decía es posible iniciar un camino diferente

y un camino que en todo caso y a todo lugar se alinee con los trabajadores y trabajadoras en lugar de con la patronal y esos caminos empiezan a desbrozar y la diputación foral de gipuzkoa lo hace cuando media para desbloquear el conflicto de las residencias y centros de días se alinea con los trabajadores y se encuentra de frente a adegi

el convenio para sus trabajadores y trabajadoras a través de una negociación seria de una negociación rigurosa no de lo que en otros términos

con los sindicatos en la mesa sectorial de la función pública mila esker eskerrik asko

de las soflamas entre gritos del señor matute yo voy a hacer un par de consideraciones un par de comentarios respecto a su

alguna cosa que se dice en su justificación decía el señor

lo expresa en la justificación de su proposición no de ley que ciertamente los ataques contra el empleo y las condiciones laborales son un problema social de primer orden se dirigen contra el conjunto de la sociedad en esto no estamos de acuerdo no creo que sea un ataque contra el conjunto de la sociedad sino que son sobre todo

en los últimos tiempos ataques y recortes sociales contra los más débiles de la sociedad por otro lado

solidaridad y apoyo a determinados trabajadores o que nos anime a manifestarnos en una serie de manifestaciones

lo cierto es que no hay cosa más reaccionaria

por mucho que se envuelva en la bandera del progreso no hay cosa más reaccionaria que lo que ustedes plantean

eso de sin aceptar ninguna ingerencia externa y dando prioridad absoluta a lo que acuerden los agentes de este país por encima de las imposiciones del estado esto es un disparate

durante el día de hoy es lo más regresivo y reaccionario que hemos escuchado durante el día de hoy

toquen a los demás pero no nos toquen a nosotros esta es la postura de eh bildu y esto es lo más reaccionario que hay por mucho que ustedes se envuelvan en la bandera del progresismo es insolidaridad pura y dura de hecho

este de los nacionalismos exaltados que abandera eh bildu

toquen ustedes a los demás forma parte del mismo motor ideológico que empuja recortes sociales contra los más débiles es básicamente

protejamos lo nuestro que ataquen a los demás y que se vulneren los derechos de los más débiles porque no son de los nuestros esto en el siglo veintiuno es lo más reaccionario que hay lo más reaccionario que hay en esta cámara es ese discurso y es ese grupo parlamentario que se llama eh bildu

absolutamente reaccionario toquen ustedes a los demás nosotros estamos aquí en nuestras fronteras vamos a salvaguardar lo nuestro pero

y yo que pensaba siempre que la izquierda fue internacionalista pues lógicamente no cuando se envuelve en el nacionalismo esa mezcla de nacionalismo de proteccionismo y de sálvese quien pueda salvémonos nosotros eso es lo más reaccionario que hay lo cierto es que

una crisis económica durísima estrecheces presupuestarias recortes sociales contra los más débiles sobre todo reformas laborales para facilitar y abaratar el despido despidos de trabajadores eres cierres de empresas en definitiva

una enmienda de totalidad al planteamiento profundamente reaccionario que nos ha traído

lo que planteábamos es que este parlamento muestre su solidaridad y apoyo a todos los trabajadores afectados en los últimos tiempos por la pérdida del puesto de trabajo a todos los ciudadanos afectados por los recortes sociales impulsados por uno u otro ámbito por uno u otro gobierno

unas condiciones de trabajo y de vida dignas y planteábamos en el segundo punto instar al gobierno vasco y al gobierno de españa

a defender políticas para la creación de empleo a defender los derechos de los trabajadores

a defender los derechos sociales a detener los recortes sociales a atender prioritariamente a quienes menos tienen a proteger a los ciudadanos más vulnerables y a implementar para todo ello políticas solidarias señor matute políticas solidarias

anticrisis en lugar de políticas localistas de corta vista que no solucionan nada eso es lo que dice nuestra enmienda de totalidad políticas solidarias para salir todos juntos de la crisis solidaridad por lo tanto e igualdad plantear el sálvese quien pueda

es lo más reaccionario que se ha escuchado en este parlamento señor matute por mucho que usted nos haya gritado al oído los demás parlamentarios por lo tanto esa es nuestra enmienda de totalidad finalmente hemos llegado a una enmienda de transacción con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo socialistas

esperemos que el resto de grupos que no han enmendado también se animen a votar

buenas tardes señorías usted señor matute ha traído una iniciativa

por la forma en que estaba redactada y porque conoce usted perfectamente la correlación de fuerzas

que siendo proponente tampoco ha buscado ningún tipo de acuerdo presumiblemente porque a la vista de las enmiendas usted mismo era conciente de que las posibilidades de acercamiento estaban bien alejadas

y estamos con los trabajadores que han perdido su trabajo con los que lo conservan a condición de perder muchos derechos

con los trabajadores en definitiva sean vascos o no por ejemplo los de caprabo filial de eroski que también se van a la calle no son de aquí pero son trabajadores

por lo tanto nosotros respetamos cómo no la iniciativa el punto de vista que la respalda y la posición que mantienen pero verá tradición y cultura la de los socialistas las instituciones

son de trabajadores son de empresarios y por lo tanto entendemos que un pronunciamiento tan parcial no hace honor al carácter que tiene que tener

por esa razón nosotros tenemos serias dificultades para suscribir en los términos que usted plantea su iniciativa porque usted lo ha dicho

y ha puesto de manifiesto que tampoco la economía productiva no ha sido cosa de los empresarios es decir

las clases populares unos y otros y por lo tanto las dificultades que hoy afloran en el tejido económico vienen como usted bien ha dicho porque

no crea que no hay coincidencia y concordancia lo que pasa es que efectivamente hay cuestiones de poso político e ideológico que hacen inalcanzable los acuerdos en esta materia

nosotros hemos apelado en nuestra enmienda a la constitución de la mesa de dialogo social por qué

son de esa enjundia son realmente problemas que hay que acometer en conjunto

no puede ser una salida digamos parcial o solo de una parte

escapan digamos a la mera voluntad o a la mera determinación tienen un alcance casi inaprensible inabarcable

en una situación en la que las instituciones la clase política la actividad política está en descrédito como es bien sabido la única manera de

precisamente una fuerza conjunta y consensuada eso no es fácil nosotros no entendemos ni creemos por esto que una mesa de dialogo social por sí misma

pero es un ámbito donde el esfuerzo y la comprensión de los problemas de una y otra parte

algún resultado y hablamos además de la mesa de dialogo social porque este es el ámbito

tenemos un consejo de relaciones laborales existe esa mesa que habrá que convocar en algún momento

no se van a operar sortilegios de ningún tipo pero solo por usar el gentilicio vasco

lo que verdaderamente opera y es eficaz es la voluntad el afán las ganas de llegar alguna parte aunque eso no vaya a resolver por sí mismo las cosas

por nuestra parte no y es más estamos muy contentos de que estén aquí presentes

que alguien que será

que además de las movilizaciones hay que construir alternativas eso cuesta un poquito más ha hablado también ha mencionado ha anunciado

es verdad que algunos lo considera periclitado pero algunos de sus análisis no han perdido vigencia y uno de sus alumnos

tiene también algún texto fundamental como el de la enfermedad infantil yo creo que se debería interesante que hicieran enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo lectura de todo eso por eso nosotros en la búsqueda de ese consenso

se junte se reúna a poder ser con todas las fuerzas sociales y los agentes económicos y a partir de ella realmente se puedan atisbar al menos algunos paliativos a estos problemas que hoy tenemos no van a ser la solución

y por último decir que usted hace una censura del gobierno vasco actual pero me llama la atención el hecho de que usted que ha apoyado un gobierno del mismo signo durante diez años

y con tanta animadversión nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen

legebiltzarkideok arratsalde on las últimas cifras son sin duda demoledoras el paro se ha incrementado sustancialmente en euskadi

hoy tenemos que ser conscientes que su azote aún puede ser duro muy duro y más allá de las graves consecuencias económicas esta crisis está generando desmotivación en personas y familias por ello es absolutamente necesario trasladar nuestra solidaridad y apoyo a todas aquellas personas que sufren de forma más directa las consecuencias de esta situación sin embargo desde euzko

que el amparo que esas personas realmente merecen es responder trabajando

no es momento solo de denuncia no es momento solo de protestas la situación ya la conocemos el diagnóstico está hecho y la receta solo puede escribirse con el apoyo de todos y de todas mediante el diálogo

la negociación encontrando soluciones compartidas poniendo a las personas en el centro de la solución para ello desde euzko abertzaleak definimos como herramientas imprescindibles contar con un plan de empleo que aborde medidas concretas y ajustadas

entendemos que calificar como estos días se ha hecho de parodia de mal gusto a los planes de empleo así en general

cuál es la alternativa dónde están los planteamientos alternativos serios para dar solución a esta situación qué oportunidad damos a las soluciones si las descalificaciones anteceden a la presentación de las medidas concretas es fácil señor matute

a la solución que es tremendamente compleja me refiero a que es muy sencillo llenar el camino ese camino suyo de

de soflamas vacías y cuestiones sin respuesta pero eso es responsable ahí tiene usted esta pregunta besterik ez

gracias señora presidenta antes de entrar a hablar de la iniciativa y de la intervención de presentación de la misma voy a referirme en primer lugar al desempleo

es probablemente lo único que todos compartimos hoy aquí

que debe de afrontar y resolver la economía de nuestro país en la actualidad españa y euskadi tienen una de las tasas más elevadas

que todas las instituciones debemos poner en marcha medidas que en primera instancia detengan la sangría y ese incesante goteo de personas

pero también es evidente que esta situación no surge de forma espontánea que existen unos antecedentes unos precedentes y unos responsables que no se pueden obviar y no es que queramos eludir responsabilidades no desde luego

desde el partido popular y desde el gobierno de mariano rajoy si algo no se ha hecho es gobernar a base de comodidad

a base de caer bien sino lo que hay que hacer y lo que se ha hecho es un ejercicio de realismo político un instrumento imprescindible para llevar a cabo un análisis riguroso de la coyuntura actual porque el gobierno encontró una economía en situación agónica

y con necesidad de aplicarle un tratamiento terapéutico de choque la lista de datos negativos acumulados y heredados por el actual gobierno de españa serían

sino de ponerse a trabajar entre todos para taponarla suturarla y cicatrizarla y para recuperar la maltrecha economía del país y la senda de un crecimiento económico y la creación de empleo

llevó a cabo los ajustes económicos más importantes probablemente de la democracia un conjunto de reformas estructurales aprobadas y aplicadas por el gobierno aún reconociendo como decía la dureza de las mismas pero que son absolutamente imprescindibles el esfuerzo realizado

que merece ser puesto en valor y debe de ser reconocido pero sobre todo quien mayor reconocimiento merece ha sido el conjunto de la ciudadanía por el sacrificio colectivo que ha tenido que soportar en febrero del año pasado se aprobaba la reforma laboral

porque la situación de nuestro mercado laboral estaba marcada por la inflexibilidad y la rigidez

flexibilidad y gracias a este marco laboral hay empresas que van a venir a nuestro país y van a crear puestos de trabajo y además

fundamentalmente lo que quiere es sentar las bases de una recuperación porque si con anterioridad a la reforma se necesitaba crecer a un ritmo de un dos por ciento para crear empleo

no se puede crear empleo sin embargo con la entrada de la nueva reforma se generarán puestos de trabajo en cuanto haya un crecimiento del cero coma cinco por ciento del pib y concluyo

que decía que la reforma laboral de españa marca el camino del resto de europa y que la economía española se está ajustando de forma extraordinariamente rápida y es más otros países están siguiendo

señor matute yo no sé si es que usted echa de menos a chávez y nos ha venido hoy aquí a lanzar un discurso de despedida

como si en un mitin estuviéramos y además diciéndonos que nos suena conocido mire yo había coincidido en esta cámara sí en otros debates y debo de reconocer que es un experto su libro a usted el capitalismo y la crítica al capitalismo le sirve para todo para todo da igual de lo que se trate da igual de lo que estemos hablando la crítica al capitalismo le sirve para todo

y el gran destructor de empleo de este país se ha olvidado de otro ismo que ha sido el gran destructor de empleo de este país

usted no la haya mencionado que ha sido la actividad criminal de eta porque no nos vamos a referir

a la destrucción de puestos de trabajo a los centenares de empresarios emprendedores en definitiva de generadores de puestos de trabajo que por la presión ejercida mediante el chantaje o la extorsión y ante el riesgo que ello suponía para su persona y su familia

y trasladarlos fuera de euskadi desde luego el terrorismo ha sido un verdadero obstáculo para la captación de nuevas inversiones de nuevas oportunidades empresariales y por tanto laborales

vasca y además no es una afirmación en sí están absolutamente cuantificados todas estas pérdidas y todos

que su grupo sigue sin condenar y ustedes solicitan la adhesión a la manifestación del próximo día nueve y nos parece legítimo que la ciudadanía

si desde luego si desde la diputación de gipuzkoa y ante manifestaciones contra el puerta a puerta ustedes mostrarán

esa misma adhesión a todas las manifestaciones

pero le vuelvo a decir hay manifestaciones a las que su grupo jamás se apuntó y yo solo le digo usted ha dicho mirando a los ojos a los trabajadores pues yo le digo que mire

nunca se apuntaron a esas manifestaciones y desde luego nosotros solo queremos expresar

y apoyo con los trabajadores está absolutamente fuera de toda duda que desde luego las reformas que se han hecho y que seguro que mañana

se han hecho precisamente para conseguir recuperar como decía la senda del empleo para conseguir recuperar la economía española

a euskadi a crear empleo y por lo tanto nuestra solidaridad y apoyo con los trabajadores con ese primer punto de la enmienda transaccional está fuera de toda duda

el apoyo a ese segundo punto de la enmienda transaccional de que se convoque esa mesa de diálogo social porque como decía el señor itxaso aquí está nuestro marco de decisión porque de verdad que de la misma forma que usted siempre recurre al capitalismo también un recurso

el marco propio de decisión como si eso fuera la solución para

porque como también han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra es tiempo de ponerse a trabajar es tiempo de trabajar
y no de gritar nada más y muchas gracias eskerrik asko

pero sí haré en primer lugar una consideración me gustaría que en esta cámara

tuviera el mismo celo a la hora de exigir que se centren en el tema para todas las personas porque estamos relativamente cansados

este portavoz no tiene ningún problema con escuchar lo que le ha dicho el partido popular porque además ha salido a dar cumplida repuesta lo que no entiende es el doble criterio de esta presidencia cuando la semana pasada ante

se nos exige que nos vayamos al tema y hoy matute jauna mesedez zurera

ser retirada la palabra me centraré en pocas cuestiones la primera se la voy a aclarar a la señora llanos es cierto que hemos coincidido poco en esta cámara también es cierto que para mí uno de los problemas si no el problema fundamental es el capitalismo probablemente para usted no lo sea pero eso

cuál es el germen de muchas de las precariedades que vive este país

en realidades diferentes planteaba que por qué no íbamos a las manifestaciones y que por qué mi formación no condena la violencia

por eso la ley de partidos pese a su voluntad quizás no ha podido ser aplicada contra esta formación política sigan con la retahíla cuanto tiempo quieran pero desde luego

no sé si quizás con mucha más antelación que usted pero más allá de eso que en el fondo sería una carrera bastante estéril por ver quién es más puro o quién es más listo

si el diagnóstico como decía el representante del partido nacionalista vasco parece

en toda la gente y en los miles de daños colaterales de la función pública también y también

de qué ha servido esa mesa de diálogo social que hoy invocan como solución si esa mesa de diálogo social ya estaba en la anterior legislatura

nosotros no venimos aquí a hacer soflamas o solo a mostrar una indignación que también

le ha hecho imperceptible eso nosotros venimos aquí a denunciar por supuesto y nosotros tenemos una visión

diferente a la que ustedes tienen pero no por ello menos legítima o por lo menos no tan poco legítima cuando la ciudadanía está reclamando

no sé si con un tono más o menos airado pero en cualquier caso eso mismo insisto cuál es la respuesta que puede dar la mesa de diálogo social si no ha sido capaz de hacer nada y nosotros apostamos por modelos tradicionales apostamos por mantener las treinta y cinco horas

el trabajo porque ustedes hablan de creación de empleo pero se olvidan de repartir el trabajo ustedes hablan de competitividad pero se olvidan de que este país ya es productivo que los es tanto al nivel de alemania por ejemplo y que lo que aquí hay es un problema de mala gestión

en mucha mayor medida y decía un representante del partido socialista que no era objetivo de esta iniciativa concitar adhesión es un problema que no se conciten adhesiones pero no es nuestro problema se lo tendrán que explicar a la ciudadanía o quien quiera y quien tenga ganas tendrá que explicar a la ciudadanía por qué

por qué apoyar las manifestaciones que van a tener lugar en iruña

y apoyar el ámbito vasco de decisión es algo que no merezca su respaldo no voy a perder yo mucho más tiempo citaba lenin el infantilismo infantil de la izquierda yo puedo coincidir con usted

que lenin citaba probablemente no estaríamos en este parlamento y estamos intentando también hacer un camino transicional también desde aquí en cualquier caso

cuando habla del derecho a las nacionalidades a la autodeterminación o léase también a ernest mandel cuando habla de clase en sí o clase para sí ayude mucho más a definir la identidad de una formación política en torno a las ideas que en torno a las siglas que quedan caducas obsoletas y a veces caídas y termino ya con una

a upyd en otras intervenciones no por ir relegando a mí no me preocupa que ustedes sean uno o que sean dos o que sean veinte prefiero que sean uno pero también es sentido al partido popular yo creo que ustedes venían a este debate y voy a citar

ustedes venían a este debate probablemente con unos atrevimos muy sólidos para la señora del partido popular y probablemente para usted que nosotros somos el brazo político de eta

y yo venía a este debate con la sensación de que usted era una persona inteligente concluido este debate yo llego a una certeza

estábamos equivocados eskerrik asko

gracias presidenta no le voy a contestar señor matute a sus insultos únicamente quiero recordar la enmienda de totalidad que hemos presentado y lo que nosotros

en esta enmienda de totalidad hablamos de defender políticas para la creación de empleo defender los derechos de los trabajadores

detener los recortes sociales atender prioritariamente a quienes menos tienen proteger a los ciudadanos más vulnerables e implementar políticas solidarias y políticas

localistas de corta vista que no solucionan nada esto es lo que siempre hemos defendido en estos cinco años de vida y esto es lo que seguiremos defendiendo y quería añadir algo y por eso he bajado a la tribuna algo que no he comentado antes

respecto a las huelgas o manifestaciones que puedan convocarse que nosotros las respetamos absoluta y profundamente aunque lógicamente no vamos a sumarnos a aquellas que nos señale el señor matute respeto absoluto a todas aquellas manifestaciones

se convoquen los trabajadores tienen todas las razones seguramente y todo el derecho del mundo a convocar las manifestaciones y las huelgas también que consideren

de reformas laborales injustas de despidos o de eres una cosa es esto y otra cosa es

un discurso de corta vista un discurso proteccionista un discurso como el que ha realizado el señor matute

esa enmienda de totalidad y por eso votaremos esta enmienda de transacción que creo que es perfectamente razonable y apoyable por todos los grupos de esta cámara excepto

bueno básicamente decir que en esas movilizaciones habrá gente socialista casi seguro lo que pasa es que ustedes planteaban

de esta institución de este parlamento y creo que hemos explicado por qué razón declinábamos o rehusábamos el ofrecimiento decirle en todo caso que sí que es verdad que

efectivamente eso no es un propósito general porque hoy dentro del seno del capitalismo hay dos grandes corrientes de pensamiento económico que están contrapuestos es decir que por lo tanto

cuando están enfrentadas dos corrientes de pensamiento económico que plantean soluciones y alternativas distintas en este momento yo creo que usted aunque no sea procapitalista

permítame decirle que no le he recomendado a usted ninguna lectura porque presumo que es leído simplemente he recordado

pero quiero recordarle como acabó aquello de la primavera de praga que fue

señor matute me ratifico no en lo del tono

en la segunda parte desde mi punto de vista pero realmente considero soflamas vacías y arengas huecas sin solución alguna

algunas cuestiones primero yo había tenido dificultades y tengo algunas dificultades

con los carteles que los he leído atentamente he tenido dificultades para saber quién convocaba también he tenido dificultades

o venía aquí esperando algunos argumentos

desarrollase sobre esta cuestión sobre la manifestación

para que desarrollase esos argumentos y no he oído ninguno cero argumentos

a manifestación me quedo con el planteamiento de la mesa en cualquier caso

gracias señora presidenta señor matute verdaderamente en esta segunda intervención

ha empeorado en el fondo yo creo que desacreditar a otros parlamentarios

de las ideas o de las manifestaciones que hagan no me parece lo más adecuado y ustedes lo hacen porque creen que tienen el monopolio

de lo que está bien y de lo que está mal de lo que conviene y de lo que no conviene de lo que hay que hacer en cualquier orden

y a quien no comparta lo que ustedes dicen no ya que están equivocados que es perfectamente respetable que usted lo diga porque evidentemente

y por eso nos votan distintos ciudadanos a las distintas opciones políticas se puede criticar y se puede discrepar pero lo que no se puede hacer es desde luego lo que usted hace con aquello con lo que no está de acuerdo que es desacreditarlo total y absolutamente creo que no es hacer política las ideas como se le ha dicho aquí las propuestas se combaten desde el punto de vista del razonamiento no desde las soflamas se combaten desde dar argumentos no desde la desacreditación del que no piensa como tú

si no dice lo que yo digo y no defienden lo que yo defiendo entonces no solo está equivocado sino que además no tiene derecho a defenderlo creo que eso no es hacer política y miren no es una matraca es una realidad que nunca

es hacer ver como que el terrorismo en euskadi nunca existió y yo

porque tenía total total relación con el tema que estábamos debatiendo por qué

a efectos de empleo a efectos de fortaleza es muy importante a la hora de que cuando las cosas vienen mal cuando vienen situaciones adversas desde el punto de vista económico

cuando existe una fortaleza de empleo cuando existe un entramado de empleo fuerte se combate mejor y desde luego euskadi hubiera estado en una posición de salida infinitamente mejor

porque mire los documentos no me los invento yo están aquí en un documento oficial de la ertzaintza y que la pérdida del terrorismo a supuesto

una pérdida del veinte por ciento anual del pib

veinticinco billones de las antiguas pesetas si usted cree que eso no tiene relación con la destrucción del empleo con estar en una mejor posición a la hora de afrontar la crisis económica es que desde luego yo

absolutamente equivocado y yo sin más reiterar que estoy de acuerdo con la iniciativa que ha planteado porque creo que esa es la senda la senda de trabajar

y la senda de entre todos poner las bases como decía para más haya de protestar que es absolutamente legítimo y que desde luego que nosotros respetamos que todos los ciudadanos lo hagan más haya de eso ponerse a trabajar para recuperar